y esto por qué porque tenemos un gobierno cuya frase fuerza cuyo eslogan cuya frase pórtico es compromiso con las personas

así como con otras iniciativas de base social que están esperando a que de una vez por todas

de centros especiales de empleo y el gobierno no solo no cumple con estos ciudadanos sino que no cumple ni siquiera con sus propios compromisos como tendremos ocasión de ver y por qué no existe un registro de centros especiales de empleo hagamos un poco de historia para centrar el tema y el objeto de este debate

se registró la moción el diecisiete de diciembre y se trató en esta cámara el trece de febrero de dos mil catorce qué decía entonces aquella moción

con la participación de sindicatos y agentes y con efectos retroactivos a uno de enero para quienes se inscriban este año en orden a la captación de ayudas que con cargo al ejercicio dos mil catorce puedan obtener dichas entidades bien

de junio de dos mil catorce se le preguntó al consejero del ramo a ver qué pasaba que no se cumplía con este acuerdo a punto de finalizar el periodo de sesiones

consejero entonces a la sazón y hoy flamante alcalde de bilbao nos decía

que hacía falta más tiempo porque si se quiere hacer de la mejor manera es mayor que el establecido por el acuerdo al que hemos hecho referencia

y en ese marco jurídico propio establecer la normativa de los centros especiales en fin y que sin un marco jurídico cierto esto dificultaba la tarea posteriormente

el gobierno cuando le preguntan a ver qué pasaba con esto dice que es muy complejo elaborar esto es del veinte de octubre del dos mil catorce unos meses después que es muy complejo elaborar un registro sin la referencia normativa de la ley por lo que establecer límites temporales se nos hace difícil en todo caso la aprobación de la normativa se hará cuando se hayan desarrollado todos los mecanismos que garanticen el consenso posible en esta materia y estimamos que no debiera pasar del primer

tal y como se emplaza la enmienda estamos en fase de contrastar este segundo borrador con los diferentes agentes afectados etcétera etcétera etcétera bueno yo creo que el gobierno tiene como libro de cabecera

el derecho a la lentitud el derecho a la lentitud que por cierto hablando de derecho nos presenta un borrador hace ya un año nos presenta un borrador hace un año

todas las cuestiones referidas son las mismas que plantean decretos de otras comunidades autónomas naturaleza objeto definición alcance en fin sin embargo por ejemplo no define el concepto de centro especial de empleo que sí por ejemplo define el decreto de la comunidad de aragón doscientos doce barra dos mil diez

que abre los registros y lo hace sin darse ningún pote tampoco plantea la posibilidad de recursos administrativos

como sí hace el decreto noventa y seis barra noventa y siete de la comunidad de madrid o por ejemplo sobre el cambio de titularidad como regula el decreto dos barra dos mil quince de la comunidad autónoma de la rioja es decir que para llevar tanto tiempo para

en el tiempo de esta manera sin cumplir acuerdos parlamentarios la verdad es que no han hecho un texto tan avanzado ni tan

pero sinceramente yo prefiero que el gobierno apruebe el borrador tal y como está a que diga que lo quiere mejorar gracias a las aportaciones que aquí hacemos porque la verdad es que esto

sobre la cuestión de las ayudas públicas sobre la cuestión de las ayudas públicas es por esto que ponemos también la moción que presentamos hoy

insta al gobierno vasco a que en el plazo de dos meses cree el marco administrativo para la calificación y registro de los centros especiales de empleo con la participación de sindicatos y agentes

que durante el ejercicio formalicen su registro con efectos de uno de enero y podrán ser beneficiarios y con derecho a las mismas con independencia de que las ordenes subvencionales se publiquen antes inscripción por qué porque creemos que esta es una cautela que debe ponerse porque así como

apoyo a otra moción similar no tengo tanta confianza en que el gobierno vaya a cumplir con ese acuerdo si así se dispone y con esas determinaciones

pues porque como decía antes el gobierno no cumple ni siquiera con sus propias determinaciones el dos de junio de dos mil trece

y en los objetivos a corto plazo entonces uno de ellos era impulso a la economía social con ayudas para la creación de empresas y dotación de herramientas de gestión a las empresas de este tipo bueno los centros especiales de empleo son también economía social y desde luego

señor consejero más aun tenemos los programas de reactivación

donde en la página cuarenta y tres se dice

favoreciendo la puesta en marcha de medidas que aprovechen ese potencial endógeno comarcal y local para generar y mantener empleo bueno esto también tiene que ver con las políticas locales y de paso decir que se han fumado un ejercicio presupuestario en políticas de empleo local por otra parte

en la página

se dice objetivos las personas en riesgo de exclusión precisan un apoyo especifico para aumentar su empleabilidad que en gran medida debe girar en torno al aumento de su capacitación dentro de este grupo es necesario apoyar de forma específica las personas con discapacidad

de una baja tasa de actividad luego tenemos que en el pleno monográfico de ocho de marzo de dos mil trece

de bildu en la que decía el parlamento insta al gobierno a diseñar y desarrollar ayudas dirigidas a la inserción laboral de las personas discapacitadas

y esto además queda integrado en el plan de reactivación económica o la enmienda número cien del propio partido nacionalista vasco que decía el parlamento vasco insta al gobierno vasco a reforzar el tratamiento a los centros especiales de empleo de forma específica y articular medidas de apoyo y fortalecimiento

esto lo decía también el partido nacionalista vasco pero luego tenemos

porque por documentos documentos ampulosos con una nomenclatura que habla de objetivos de ejes de líneas de actuación pues la línea de actuación

y fomento del empleo bueno no será porque el gobierno

proclamas y exhortos en fin

pero cuál es la realidad a día de hoy la realidad a día de hoy es que dos años después tenemos que volver a presentar una moción en términos parecidos que salvaguarde

y derechos de aquellas iniciativas que pretenden convertirse en centros especiales de empleo que a día de hoy no lo pueden ser a falta de registro y para que de una vez por todas puedan también

tengo más la impresión de que el gobierno va a ralentizar el trámite para hacer inviable incluso esta pretensión el señor consejero terminaba su intervención el día pasado con ocasión de la interpelación que da lugar a esta moción diciendo que bueno que el registro

es un instrumento y que lo importante son los centros especiales de empleo que requieren una atención prioritaria pues bien yo lo que le digo señor consejero es que aquí hay colectivos que se merecen y tienen derecho también a esa atención prioritaria y por lo tanto

hagan operativo ese registro de centros especiales de empleo para que puedan recibir también esos que hoy no están operando esa atención prioritaria señor aiartza yo bueno lamento no haber podido llegar a un acuerdo con usted falta de credibilidad en sus planteamientos sino porque usted está en la bancada que apoya al gobierno y a la vista de estos antecedentes el gobierno no nos ofrece ninguna credibilidad

en presencia además de interesados y de personas que aspiran de una vez por todas a que este registro esté operativo y puedan formalizar su inscripción y operar en el mercado de centros especiales de empleo como no tenemos esa confianza

no he llegado a un acuerdo con usted como le digo no porque resulte difícil de acordar con usted sino porque en este caso está defendiendo cómo no

activas de empleo la verdad es que no nos ofrece ninguna confianza lo hubiera querido pero realmente esta es una moción para decirle al gobierno que realmente no se puede seguir amparando en todo ese

que plantea claramente cuál es el marco normativo que es preexistente que viene con leyes básicas del estado que dicen cómo tienen que ser este tipo de cosas y que por otra parte en territorio común esto se ha hecho

sin mayor dificultad solo había que haber cogido haber hecho un análisis comparado de qué otros decretos regulan este tipo de instituciones y haber sacado pero es que el gobierno se está demorando

ponga en marcha los centros especiales de empleo eskerrik asko itxaso jauna

mixto de gestión de itinerarios ocupaciones y de empleo buscando generar oportunidades laborales efectivas para las personas con discapacidad en sentido amplio ha sido un modelo que ha sido siempre visto desde otras partes del estado que adoptaron otro modelo de desarrollo como una referencia en cuanto a los resultados de empleabilidad que lograba

porque siempre ha contado con una base fuerte una base asociativa que promovió esas primeras iniciativas empresariales y que hoy las sigue promoviendo conformando

desde el reconocimiento social el reconocimiento de nuestra ciudadanía hasta la constatación del reconocimiento en esta cámara en este sentido sin ir más lejos los positivos comentarios

ahora mismo puedo recordar las intervenciones de miembros del gobierno actuales y anteriores de portavoces parlamentarios como la señora llanos o de usted mismo señor itxaso

presenta la tasa junto con navarra más baja de desempleo en personas con discapacidad en relación con el estado español

a la cabeza en el empleo de colectivos con discapacidad con mayores dificultades de inserción

a la acción modélica de estas empresas no tengo ni la más mínima duda de que esta cuestión tan seria tan importante nos preocupa a todos nos preocupa a todos los grupos

es una preocupación compartida ya que hablamos de políticas activas de empleo hablamos además de personas discapacitadas hablamos de inserción laboral hablamos en definitiva de auténticos proyectos de vida

cuando nos traslada que nuestras instituciones nuestro país ha dado muestras suficientes repetidas veces de tener una especial dedicación a estos centros y a las personas con discapacidad

para su integración en el empleo y siempre pensando y actuando para mejorar pensando y actuando con la mejora constante en nuestra brújula

y hoy nos encontramos tratando esta moción consecuencia de la interpelación que en el pasado pleno de control del dieciséis de octubre usted realizó señor itxaso

como titular de esta iniciativa ya nos hacía dos

sobre usted mismo lo entendí así no que aquella interpelación

convirtiendo en esta moción cierto hoy estamos aquí tratándola

que su discurso y le cito puede parecer propagandístico electoral cierto y no es que pueda parecer o parezca sino que es propagandístico y electoral aquel discurso y el de hoy

usted señor itxaso nos quiere trasladar inicialmente una imagen y le vuelvo a citar pero lo cierto es que el gobierno sobre esta materia no ha hecho nada y

decía efectivamente es cierto que hoy estamos aquí y es cierto que su discurso es de propaganda electoral

utiliza unas muy concretas herramientas lo normal a nuestro juicio hubiese sido que nos aportase algunos datos objetivos algunos ejemplos significativos

datos documentales pero no más allá algo algo pero no

solamente retórica solo nos aporta retórica

cimenta esa falsa imagen en tres ideas las políticas activas del empleo

nos lo ha dicho en repetidas ocasiones son un hijo no deseado del partido nacionalista vasco y del gobierno

un símil no adecuado pero nos lo ha trasladado en diferentes ocasiones

otra cuestión otra idea la parálisis por la observación hoy nos hablaba también de elogio a la lentitud de proclamas y exhortos que no llegan a ninguna parte

ciertamente pero en otras ocasiones de intenciones no confesables usted sabe que esto que dice no es cierto y tampoco es justo usted sabe que esto que dice es pura propaganda

es que se está trabajando mucho y bien datos ciertos decreto diecisiete barra dos mil diez ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral ayudas a las empresas de inserción ayudas a las personas emprendedoras dos mil quince acuerdos y convenios con cooperación con instituciones organismos y universidades ayudas para las acciones locales de promoción de empleo dos convocatorias consecutivas sin interrupción convocatoria de ayudas destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas

por el empleo tres iniciativas una por cada territorio convocatoria de ayudas

para el empleo en colaboración con lanbide proyectos formación para personas desempleadas

y las específicas en el ámbito de la discapacidad subvención para contratación indefinida de personas con discapacidad en empresa ordinaria ayudas a centros especiales de empleo mantenimiento y creación de empleo unidades de apoyo a la actividad profesional en centros especiales de empleo datos ciertos esto son datos ciertos con buenos resultados en algunos casos con excelentes resultados en otros se está haciendo mucho y se está haciendo bien esos objetivos

todas estas acciones han mantenido o incrementado su dotación económica desde nuestra incorporación en todas ellas la mejora de la gestión y reconocida por la mayoría de las entidades se han recortado los plazos de ejecución se han adelantado las fechas de las convocatorias y además se han planteado nuevos programas en los que las necesidades de las personas con discapacidad en su conjunto han sido específicamente consideradas

para el desarrollo del servicio de centros de empleo en colaboración con lanbide o la convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo

para colectivos en especiales dificultades

es el de las personas con discapacidad y en los tres territorios volviendo a la moción cierto es que más allá de los fuegos de artificio de la interpelación del pasado dieciséis y si desbrozamos esta podemos concluir que al sailburu se le trasladaba única pregunta cuándo van a crear el registro para centros especiales de empleo esa era la única pregunta que pudimos sacar en claro de esta interpelación a lo que el sailburu

dejando constancia de los pasos que se habían ido dando en la elaboración de este decreto su paso y aprobación por el consejo de administración de lanbide el doce de julio y la previsión de la firma de la correspondiente orden para el diecinueve de octubre

empezará la tramitación como disposición de carácter general y hoy hoy ya sabemos que ciertamente se ha firmado esa orden el diecinueve de octubre también esto es algo cierto credibilidad de este gobierno

en todo este proceso el gobierno está teniendo la continua colaboración del tercer sector con las aportaciones de las entidades que trabajan a favor del empleo de las personas con discapacidad este gobierno sigue considerando que el desarrollo de este decreto de registro de centros especiales de empleo

debe ser señor itxaso solo una parte de un marco más general donde se analicen las necesidades las oportunidades y los retos del empleo por ello

el gobierno sigue trabajando para ofrecer un marco normativo que ofrezca respuestas a las conclusiones de ese análisis global eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta egun on guztioi bien

como ha dicho el señor itxaso una moción relativa a la creación del marco administrativo de registro de los centros especiales de empleo y la verdad es que volver a debatir la iniciativa

es fruto de algo que se puede aplicar a este gobierno y que se resume en una frase muy popular que es esa de consejos vendo que para mí no tengo porque estamos ante un gobierno

con relación a lo que tienen que hacer otros pero absolutamente displicente con sus tareas porque tengo que recordar como se ha dicho aquí que hace un año

estábamos debatiendo sobre este mismo asunto y aprobamos una iniciativa que tenía por objeto precisamente la creación de ese registro de los centros especiales de empleo y hoy

y solicitando lo mismo y la segunda cuestión es algo también consustancial a este gobierno que es experto

en la denuncia constante del incumplimiento del estatuto en la petición de más transferencias pero que es poco aplicado en el ejercicio de las múltiples transferencias que sí que sí tiene en su poder es verdad por mucho que algunos digan aquí que las políticas activas de empleo cuando se reclamaban se reclamaban de boquilla

y tuvo que ser un gobierno no nacionalista el que finalmente asumiera dichas competencias y en el ejercicio de las mismas pues no se están aplicando precisamente y esta iniciativa que hoy se trae aquí

en otras comunidades autónomas la competencia sobre las políticas activas de empleo llegó muchísimo antes y en ejercicio de las mismas estos registros los tienen aprobados desde hace tiempo en algunos como en la comunidad de madrid ya desde el siglo pasado aunque suene

es verdad que se ha dicho aquí lo dijimos en su momento y hay que reiterarlo que las dificultades de empleo han afectado a todos los ámbitos

al ámbito de las personas con discapacidad aunque es verdad que las tasas de desempleo son inferiores y es verdad que son inferiores incluso

incluso en aquellas personas que tienen más dificultades de inserción laboral

como dije en ese momento y quiero reiterar ahora que esa mayor integración es gracias a la importante labor que en euskadi han desarrollado la iniciativa social

como se dijo aquí cuando se sustanció la interpelación cuando se habla de empleo de las personas con discapacidad y de centros especiales de empleo es evidente que hay que empezar por hablar de la lismi de la legislación básica en la que aparecen definidos

son esos centros aquellos en los que al menos el setenta por ciento son personas con discapacidad y que pueden tener carácter público o privado y ser con o sin ánimo de lucro la normativa de desarrollo está recogida en el real decreto

se establece que para la creación de esos centros es necesario la obtención de la calificación por la administración y su posterior inscripción en el registro de centros de servicios públicos de empleo estatal o en su caso en el que corresponda a las comunidades autónomas

también dijimos entonces después del real decreto mil cuatrocientos cuarenta y uno barra dos mil diez

se establece que a partir de ese momento es decir a partir de enero del dos mil once a partir de que entrara en vigor el traspaso

competencia de nuestra comunidad es decir concretamente de lanbide y lanbide es el que tiene que realizar ese registro de centros especiales de empleo y es el que los está

en este momento según el consejero a través de la dirección de activación laboral

hace un año como decía antes se trató en esta cámara la creación de este registro y lleva casi también por lo que se ha dicho aquí mucho tiempo el borrador elaborado se comentó entonces y se reiteró que era necesario un marco normativo de referencia pero es que ese marco normativo ya existe se lo acabo de decir

también anteriormente luego lo que queda ahora es la aplicación de ese marco normativo y transformar el borrador lo que es un borrador en decreto es verdad

aprobó la propuesta de normativa sobre la creación del registro de centros especiales de empleo y la regulación del procedimiento de calificación e inscripción dijo que se estaba ultimando la documentación inicial del expediente para su tramitación y que el diecinueve de octubre previsiblemente que ya ha pasado

la orden de inicio del procedimiento pero la pregunta que cabe hacerse es qué se ha hecho hasta ahora qué han hecho todo este año

ya lo tienen y nosotros todavía no es que otras comunidades son más capaces que nosotros desde luego más capaces no sé pero más rápidos

cuando se debatió el año pasado esta iniciativa por parte del consejero anterior se dijo que su intención era que estuviera creado en el dos mil catorce y el que llevó

en ese pleno el representante del pnv que no fue el señor aiartza

antes que hacer bien el trabajo hombre si se pueden las dos cosas hacer bien el trabajo y en unos plazos razonables porque la verdad es que

porque tardar está tardando porque el año dos mil catorce en el que iba a estar el registro se fue el consejero también se fue y el marco no llega pero es que se está yendo este dos mil quince se irá este consejero se irá este gobierno y el registro

yo creo desde luego que en este asunto se podría haber actuado con mayor prontitud y con mayor diligencia porque va a llegar como digo el final de la legislatura y el registro

va a seguir sin ver la luz y realmente creo

modelos existen experiencias existen basta con consultarlas y adaptarlas aquí creo que no es tan complicado

porque consideramos que si ya tenía su razón de ser la iniciativa hace un año ahora la tiene más todavía

es y nosotros vamos a votar favorablemente a favor de esta iniciativa pero más allá de hablar aquí lo que yo creo que hay que hacer es trabajar allí
es decir en lanbide y que de una vez esto vea la luz nada más muchas gracias eskerrik asko llanos anderea

que el primer acuerdo parlamentario es del trece de febrero del dos mil catorce

para más de un año casi para dos señor aiartza usted me dice

que yo hablo de estas cosas pero que no pongo ejemplos acaban de ponerle uno ahí hay un ejemplo

si no es lo que yo diga es que son ciudadanas que están esperando a que el gobierno se ponga las pilas lleve a cabo una acción que ni siquiera le vale el comodín del presupuesto porque es que esto no cuesta dinero se hace se habilita el registro

y me da pues de nuevo todos los datos y además otra cosa que también hacen con bastante en fin no sé

a esa constelación de centros especiales de empleo teniendo interés teniendo ganas teniendo necesidad y teniendo motivos para ello yo

el gobierno las está enterrando no he querido entrar en otras materia que no son objeto del debate pero simplemente le diré que además

con el registro de los centros especiales de empleo en orientación laboral estamos en vacío porque al gobierno se le olvidó sacar un decreto en previsión de que

habilitante para la orientación el ces le llama la atención al gobierno porque pretende suprimir el contrato de relevo en fin planes locales de empleo ya he citado que un ejercicio presupuestario con todo lo importante que es la política activa de empleo en los planes locales y comarcales entonces eso

son hechos contrastados reales y la historia es lo único que ni dios puede cambiar eso está ahí

de modificar la génesis de lo que ha ocurrido hasta ahora más ejemplos quiere está usted presente en la comisión

donde el director de servicios de lanbide decía que el registro de centros especiales de empleo de lanbide y entonces se le preguntó oiga pero hay registro no hombre es que en el orden interno pero bueno en fin nosotros le llamamos así pero no es un registro o sea fue también una explicación del camarote de los hermanos marx realmente señor aiartza

tenemos que piar menos tenemos que teorizar menos y ponernos más a la acción política que en este caso corresponde al gobierno creen ya de una vez y no anden con circunloquios porque claro

se introdujo a propuesta suya lo de que participaran sindicatos y agentes sociales bueno esto le está sirviendo

porque resulta que después de habernos informado en todas las veces que se le ha preguntado de que sí de que estaban consultando con los agentes y con los sindicatos el día pasado termina el consejero diciendo que sí que ya hoy

supongo que será una cuestión de procedimiento pero tendría que acortarse los plazos si han hablado anteriormente porque es que realmente yo no sé si han hablado con alguien porque ustedes les preguntan con quién

con algunos en definitiva no me voy a extender más creen ese registro hay gente esperando

sino extramuros de este parlamento seguro que hay otras iniciativas que lo están demandando y cumplan también aunque no sea más que por en fin por un poco coherencia con su propios dicterios con sus propios compromisos

sobre los que habla de lo que el gobierno va a hacer en esta legislatura estamos ya en el último tiempo y de este asunto no sabemos nada eskerrik asko itxaso jauna

eskerrik asko berriro señora llanos nos lanza dos preguntas

qué se ha hecho hasta ahora cómo se ha actuado desarrollado esta competencia le he dado un listado

cierto es constatable lo que se está haciendo en todo el ámbito de las políticas activas de empleo y en este ámbito específico se está haciendo eso

comentario sobre el cumplimiento de una cuestión concreta en este caso del ámbito del registro y me está poniendo en comparación un incumplimiento de treinta y seis años de una ley orgánica del estado y no no me diga

un incumplimiento de treinta y seis años de una ley orgánica del estado con unos meses en el retraso de si podemos entenderlo así porque de hecho se está avanzado en esta cuestión

no es ser exigente con unos y

no tiene comparación señora llanos señor itxaso ponerse las pilas el gobierno tiene puestas las pilas refugiarse no se refugie en ningún sitio hay ve el listado que le he leído y no le he podido leer todo

a la parálisis por la observación nos decía

textos hay una evidencia no hay parálisis no hay parálisis hay datos y hay otra evidencia que efectivamente sí hay observación

y sigue habiendo observación es nuestra brújula la determinación de las áreas de mejora nos hablaba usted también el otro día en la interpelación de una cuestión muy interesante que es la severidad de juicio

voy a ser muy severo con usted señor consejero yo creo que en esta cuestión de la severidad de juicio usted también tiene dos criterios un criterio hacia el actual gobierno ese que determina o termina sentenciando parálisis por la observación

o una medida diferente hacia el anterior gobierno hacia el gobierno lópez la señora llanos le decía le decía a usted en esa interpelación a la que usted ha hecho referencia

por qué no lo hicieron ustedes por qué no lo hicieron ustedes

que ellos también soportaban a ese gobierno y usted respondía con una cita que se la voy a leer no lo hicimos

que usted ha hecho referencia en su segunda intervención la acción política que corresponde al gobierno esa acción política que corresponde al gobierno

no lo hicimos porque había una oposición que decía que iba a gobernar desde la misma y no planteo esta cuestión isiltasuna mesedez es una cita suya vamos

con muchísima iniciativa a eso yo le llamaría parálisis y en este caso cierta porque no hicieron nada no sacaron decreto parálisis cierta por sublimación es decir se evaporaron ustedes pasaron del estado sólido al gaseoso directamente en cuanto entraron al gobierno en cualquier caso hablaba usted también de la satisfacción llegará un momento en que

nuestro grupo parlamentario ha presentado enmienda a la totalidad como sabe al texto de la moción presentado por el partido socialista y si bien coincidimos

como es conocido en estos tres últimos años la mejora de los procesos de las convocatorias existentes para el apoyo al empleo con discapacidad ha mejorado sustancialmente

y acortando los plazos de las mismas en este sentido en este ejercicio dos mil quince todas las ordenes de ayudas al empleo en la discapacidad se encuentran publicadas y varias de ellas resueltas por su totalidad resueltas en su totalidad por ello nos parece más adecuada la redacción de nuestro segundo punto

planteamiento de retroactividad que a nuestro juicio supone inseguridad

en su totalidad es decir estamos hablando de un presupuesto de lanbide destinado a personas con discapacidad de treinta y seis millónes trescientos cincuenta mil euros y que afecta que beneficia

sí señora presidenta si me lo permite desde el escaño porque voy a ser muy breve mire es que su intervención

ha sido un claro ejemplo desde qué distinto prisma ven ustedes las cosas cuando las hace el gobierno vasco a cuando las hace no ya solo el gobierno central sino incluso el gobierno vasco cuando no estaba gestionado por ustedes yo es verdad que le dije al señor itxaso

y no me podrán decir por lo menos a esta parlamentaria que no es exigente o que no lo fue en su momento con el gobierno del señor lópez y que no le echa en cara cosas al partido socialista en este momento pero es que ustedes ya les están superando es que ya les están superando porque es verdad

pero es que ustedes llevan más tiempo y siguen sin crearlo siguen sin crearlo yo creo que de verdad

porque es que hay modelos que no están ustedes partiendo de la nada no se trata de descubrir la piedra filosofal que existen ejemplos en otras comunidades que no hace falta que

que con crear una cosa parecida que permita a quien en este momento no está en el registro

poder acceder a ayudas como los que sí están ya constituidos yo creo que sería suficiente yo de verdad creo que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno y en este caso vamos yo no sé cómo será después el registro
pero creo que se conformarían con algo que no fuera tan excelente pero que estuviera hecho ya nada más muchas gracias eskerrik asko

otros centros especiales de empleo que hasta ahora no han podido solicitar esas ayudas que son muy importantes para ellos para poner en marcha su actividad y para ayudar a las personas que tienen diversidad funcional bueno pues que ahora sí lo puedan hacer prontamente y puedan por lo menos jugar
con las mismas oportunidades que el resto de centros especiales de empleo eskerrik asko zulaika

eta gainera zerga batekin con el impuesto al sol porque en estos momentos sí se puede hacer autoconsumo pero sale bastante más barato seguir con el modelo actual seguir conectado a la red

de gas o de carbón de centrales nucleares independientemente sale bastante más barato seguir en ese modelo que se basa los combustibles fósiles en ese modelo contaminante y centralizado en manos de cinco empresas que ponerse una placa en su tejado en su terraza en su jardín

comunitario sale bastante más barato en estos momentos gracias a este real decreto que es precisamente lo que busca que ponerse una placa por qué

se inventa un nuevo impuesto el denominado impuesto al sol que traducido

a un tema que podríamos entender un ejemplo que podríamos entender mucho más fácil a tener una huerta y unos tomates supone que yo le tengo que pagar

y por consumir unos tomates al estado por qué

porque hay una red de supermercados que para esa gente que no puede tener huerta y plantar y comer sus propios tomates

que les pueden dar a esas otras personas entonces yo soy un insolidario por plantar y comer mis propios tomates eso es el real decreto de autoconsumo eléctrico

excepción que se ha puesto ahora después de las alegaciones y es que si planto o consumo diez o menos tomates

solo pago por plantarlos no por que me los como muchas gracias

pero ahí no se para este real decreto

hacer todavía más difícil la posibilidad de que produzcamos y autoconsumamos nuestra propia energía por métodos renovables

además prohíben también que lo podamos hacer de una forma comunitaria volviendo al ejemplo de los tomates nos prohíben

una huerta comunitaria prohibido totalmente se prohíbe

de autoconsumo y autoproducción eso es lo que hace el real decreto y por cierto imposibilita o no recoge la posibilidad neto es decir la electricidad que podemos producir en nuestras instalaciones si en algún momento no la estamos consumiendo y tenemos sobrantes la tenemos que regalar a la red se la tenemos que regalar a iberdrola

se la tenemos que dar gratuitamente o si no nos tenemos que hacer empresarios convertirnos en pequeñas empresas

darnos de alta en el impuesto de actividades económicas etcétera etcétera

para que a nadie se le ocurra hacer autoconsumo y ponerse una placa en su tejado lehen esan dut hau mehatxu bat zela

efectivamente en lo que tiene que ver con el real decreto de autoconsumo

y creo que también conocemos la opinión de los diferentes grupos parlamentarios el trece de diciembre de dos mil trece debatimos otra proposición no de ley que también

relativa a este mismo tema aquel día el acuerdo fue respaldado por el partido nacionalista vasco eh bildu y el partido socialista de euskadi en aquella transacción aprobamos cinco puntos dos de los cuales se referían a solicitud y actuaciones al gobierno de españa

actuaciones que dependían exclusivamente del gobierno vasco desde aquella votación ha ocurrido lo más grave el real decreto ya es una realidad porque en aquel momento

el compromiso del gobierno vasco quedó solamente ahí empezó y terminó en la firma de aquella enmienda transaccional

a sus propias exigencias porque el punto cuatro de aquel acuerdo decía en el caso de que entre en vigor el real decreto mencionado el gobierno vasco analizará propuestas concretas para favorecer el autoconsumo de energía eléctrica entendíamos quienes aquel día acordamos con el grupo que sustenta al gobierno que existía voluntad y compromiso por hacer algo pero una vez más son firmas que nunca van a ningún sitio el acuerdo íntegro se remitió tal y como se pedía al congreso de los diputados al senado

y a la presidencia del gobierno de españa nada más y nada menos contándole aquel gran acuerdo que habíamos decidido algunos aquí

nada y ahí nos quedamos el trece de diciembre de dos mil trece y ahí mismo o quizás peor nos encontramos hoy en opinión de mi grupo parlamentario este es el peor escenario posible y esperamos que con el cambio de gobierno en diciembre no llegue nunca a aplicarse porque el psoe se compromete a derogar este real decreto teniendo en cuenta lo anterior y leída la propuesta original hemos realizado una enmienda

porque lo que es indudable es que todos los grupos a excepción del partido popular rechazamos el real decreto y además lo décimos claramente pero entendemos también que este parlamento no puede quedarse en el rechazo sin demandar del gobierno vasco que debe actuar

por todo ello manifestamos que efectivamente está bien como digo que todos rechacemos el real decreto que viene del temido madrid ese que tiene la culpa de todo y está muy bien el compromiso que hemos adoptado todos los grupos políticos de derogarlo tras las elecciones de euskadi pero debemos preguntarnos en euskadi qué

cuáles son los siguientes pasos a dar porque entendemos que el rechazo del real decreto debe llevar implícito una apuesta sobre una política energética concreta que es lo que a día de hoy nadie conoce

el autoconsumo energético y lo decíamos antes de que se adoptase este real decreto

con autoconsumo y de producción con autoconsumo lo decía yo misma tal y como pueden constatar en las actas de aquel debate

asociaciones empresariales sindicatos y movimientos sociales firmantes del compromiso de la sociedad a favor del derecho cívico

el grupo socialista asume en su totalidad el manifiesto y por ello

que los ciudadanos vascos quieren hechos y en temas como el de la energía el gobierno de urkullu se define por la autocomplacencia el real decreto implica que además de pagar los peajes al sistema como cualquier otro consumidor

extra por el mismo derecho a utilizar la red que el resto de consumidores a la potencia y a la energía autoconsumida y hoy al igual que el trece de diciembre de dos mil trece

entre los grupos que formamos parte de esta cámara durante la negociación de esta proposición no de ley para intentar llegar a acuerdo uno de los aspectos que preocupaba al partido nacionalista vasco

que según el partido nacionalista vasco no pagan este impuesto al sol es cierto que la normativa establece condiciones especiales para la aplicación del impuesto en las instalaciones domésticas pero la interpretación que hace el partido nacionalista vasco de esta disposición no es la acertada

cuando lo que este acuerdo lleva implícito son compromisos de actuación concreta del gobierno vasco además de todo lo dicho el real decreto va contra las recomendaciones de la comunidad europea una directiva relativa al mercado interior de la electricidad y una segunda directiva que habla de fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables el autoconsumo

es beneficioso para el mismo el grupo socialista como los grupos más entendidos en esta materia hablan de que el autoconsumo es solidario reduce el precio de la electricidad genera competencia en el mercado eléctrico

españa es el único país del mundo con una regulación de autoconsumo diseñada para evitar su desarrollo en vez de promoverlo y aunque todo lo que podamos decir sobre el real decreto

que tuviera un único punto y por tanto el partido popular se hubiera quedado solo

la autocomplacencia el gobierno vasco puede hacer más de lo que hace

podría adquirir compromisos que vayan más allá de lo que queda escrito en un papel o se firma

nuestro nivel de autogobierno permite actuar más allá de mirar a madrid para buscar al culpable de todos los males cuando el gobierno vasco no quiere actuar siempre es responsabilidad del gobierno central cuando euskadi se siente amenazada por la actuación del gobierno de españa el partido nacionalista

siempre balones fuera se habla del estatuto hablamos de las competencias eso sí el pnv es especialista en cuando le interesa sacar la cabeza en esto del autogobierno busca la forma porque existen de poder desarrollar nuestras propias competencias y en el tema de la energía también podríamos hacerlo

y en madrid hemos actuado en consecuencia pero estamos a favor de que los vascos hagamos algo en defensa de las energías renovables

que no concuerdan con las decisiones que luego toma el consejo de gobierno los nacionalistas vascos

y dicho esto qué hará el gobierno vasco para actuar en consecuencia y proteger a esos ciudadanos vascos que quieren desarrollar el autoconsumo viendo la enmienda del partido nacionalista vasco a este punto en concreto releyendo las respuestas realizadas esta portavoz a la consejería responsable

escuchando las declaraciones del lehendakari en actos concretos por mucho que nos hable del top ten de euskadi en las energías renovables que ya me gustaría que me lo explicara asistiendo a la ponencia de energía cuando se convoca y escuchando las intervenciones posteriores a los comparecientes el grupo socialista llega a una conclusión clara

se va a quedar en la crítica total al gobierno de rajoy cuando gobierne pedro sánchez será la crítica total al gobierno de pedro sánchez y de aquí

que quiere acabar con el autogobierno vasco entendemos que no es de recibo que todas las enmiendas del partido nacionalista vasco siempre vayan en la misma línea

exigimos las que no tenemos pero no desarrollamos las que tenemos eso es lo que ustedes hacen siempre dicho esto

hemos firmado entendemos que tienen puntos en los que quizás todos los grupos en uno u otro punto pudieran estar de acuerdo

rechazamos todos los grupos obviamente menos el partido popular y el resto de puntos en fin pedir que la ponencia

tampoco parece tanto pedir pedir que el ararteko se posicione en este tema como en otros muchos temas entendemos

lo que creemos es que en esto del autoconsumo como en otros muchos temas hay partidos políticos que se ponen de frente y dicen claramente lo que piensan que podemos compartirlo o no como es el caso del partido popular

no está mal y luego tenemos a otros grupos que también nos hemos posicionado cuando hemos tenido oportunidad de hacerlo

al partido nacionalista vasco que no se sabe no contesta y siempre quieren quedar en esa posición de mediopensionistas

pero cuando le pedimos muy bien vamos a rechazar esto lo derogaremos cuando podamos y ustedes qué van a hacer para actuar en la situación contraria entonces de eso nada

ya no es borrador hay una normativa clara y estamos ante una situación en la que ciudadanos vascos organizados en asociaciones competentes en este tema están pidiendo actuaciones concretas
y de lo que sabemos es que ustedes como he dicho nada de nada eskerrik asko rojo andrea mistoa

sí gracias presidenta vamos primero a escuchar qué es lo que dicen los demás grupos

en todo caso estos ataques furibundos al resto de grupos no sé si lo que buscan es que efectivamente algunos de ellos voten a favor de la iniciativa o que finalmente

voten en contra porque da la sensación de que cuando ustedes dos votan determinadas iniciativas

pero bueno en todo caso quizá si permiten la votación por puntos

ya digo que no todos pero en fin en todo caso y en relación a esta cuestión desde luego es un tema muy interesante y en relación a los cuatro puntos iniciales que

nosotros tenemos que decir que en principio veíamos bien tanto el primero como

a la retirada del real decreto y en lo que se refiere al incremento de las ayudas que ahí se señalan en todo caso

seguiremos escuchando los argumentos de unos y de otros y luego diré alguna cosa en relación a la transaccional que ustedes han firmado

al autoconsumo que es una técnica de producción de energía basada sobre todo en renovables se está produciendo un debate muy interesante sobre los problemas de fondo de la política energética el sistema energético es algo complejo donde no hay

es de hacer una política lo más equilibrada posible en la cual los costes de tipo medioambiental y económico pues sean los menores posibles el autoconsumo

tiene que tener su lugar porque lo que no entendemos es qué hay detrás

de esa negativa permanente a regular adecuadamente algo que está regulado ya en muchísimos lugares del mundo

el gobierno de españa mantiene sus postulados en relación a estas cuestiones lo que hay en el fondo es una defensa inflexible de un modelo energético que ha demostrado su fracaso un modelo energético donde se perjudica tanto al pequeño

consumidor con efectos muy perjudiciales también

además hay un problema de mentalidad esto de pagar por una cosa que uno no quiere o que no necesita que sería esa tasa

feudalismo energético es un impuesto de la edad media donde se obligaba a la gente a pagar al señor del lugar

porque el señor del lugar tenía un molino el esquema es básicamente el mismo es igual te obligan a pagar una tasa un impuesto porque existe una red de distribución

uno no la use en ese momento mentalidad por lo tanto claramente feudal el resultado es que españa sigue teniendo una política energética desastrosa y que todo lo que sea proponer

es un fracaso porque no tienen ningún pase a aceptar que determinados intereses o determinado modelo de negocio sea el eje de la política energética

además un país muy adecuado para ello esto es efectivamente lo que pensamos nosotros y se trata de unificar avances en tecnología

modelos de ciudades para producir lo que importantes agentes sociales como la fundación renovables y otros han propuesto que es convertir a las ciudades y a las zonas urbanas no solo en consumidores de energía sino también en productores

un gran papel lo que nosotros proponemos es que dentro de ese mix energético el autoconsumo tenga el máximo papel que pueda tener en términos económicos de rentabilidad y eficacia esto es lo que nosotros proponemos lo que no es razonable

impedir siempre mediante esta vía feudal medieval preliberal de poner constantes barreras de acceso tasas disuasorias penalizaciones abusivas en fin que llevamos padeciendo toda la legislatura para que el modelo productivo efectivamente se modernice al final de lo que se trata es de un modelo obsoleto esto es lo que tenemos un modelo que de una manera coloquial hemos encuadrado en ese concepto de capitalismo de amiguetes donde hay unas relaciones privilegiadas con unas empresas para las cuales es mucho más cómodo tener unas buenas relaciones con el poder político que esforzarse por competir y por innovar

a los tomates porque es el ejemplo que pusimos nosotros en el congreso de los diputados efectivamente es como si planto una tomatera

y me obligan a pagar un peaje porque hay un tendero

simplifica muy bien de qué es de lo que estamos hablando en fin por lo tanto compartimos los argumentos que se han expuesto hasta ahora en relación a esta cuestión la fundación renovables se ha dicho cosas muy interesantes en los últimos tiempos en relación a este asunto la fundación renovables afirmaba recientemente que tanto la industria como las pymes y los hogares

tomar un papel activo en el sector eléctrico pasando desde una posición pasiva de compradores de energía a productores activos y autoconsumidores de energías

el autoconsumo es un instrumento clave para la democratización de la energía como derecho ciudadano en general y no solo de los de mayor poder adquisitivo tal y como insinúa el real decreto de autoconsumo del gobierno que consecuentemente pretende gravarlo y regularlo de forma disuasoria el real decreto decía esta fundación es un desprecio

por la sumisión a los intereses especuladores del oligopolio eléctrico español en un intento de posponer la generalización de las renovables y en este caso

y el empoderamiento de la sociedad civil compartimos efectivamente todos estos argumentos perfectamente explicados por la fundación renovables a pesar de que nosotros habíamos presentado

decreto nos oponemos firmemente a él y esperamos que el próximo gobierno de españa derogue este decreto por lo tanto compartimos algunos de los puntos recogidos en la transaccional el fundamental el principal el primero de ellos

al incluirse en esa transaccional que lo que se pretendía con ellos es que esta iniciativa

se propone en el segundo punto instar al gobierno vasco a presentar en el parlamento un informe que analice las repercusiones de la mencionada normativa y las posibilidades de poder desarrollar

y la producción eléctrica distribuida pensamos que no existen competencias para ello de hecho nadie lo ha hecho hasta ahora tampoco el partido socialista lo impulsó cuando gobernó con lo cual entendemos que el partido socialistas efectivamente reconoce que no tenemos competencias para ello

y este es un debate permanente se repite cuando el gobierno de españa aprueba leyes

yo creo que lo que básicamente hay que hacer es una de estas dos cosas o cambiar de gobierno obligar a este gobierno a cambiar esas políticas concretas sino estaríamos en un proceso permanente de independizarnos todos de aquellos gobiernos que toman decisiones

pensamos que no tenemos competencias y que por lo tanto lo que hay que hacer es cambiar esas políticas o cambiar al gobierno estamos de acuerdo en el incremento de las ayudas

y en relación a lo que se propone en relación a la ponencia nosotros esperamos que esa ponencia trabaje lo máximo posible más allá de que upyd pues no está en ella porque el trabajo se nos acumula pero en fin se trata de que esa ponencia se reúna más veces y quizá allá por el mes de enero pues pueda realizar sus aportaciones

pues no sé si quizá sea algo superfluo en todo caso aquí lo importante oponernos al real decreto cambiar la política energética que se ha aplicado en los últimos años en españa cambiar esas políticas cambiar de gobierno y eso creo que es lo más importante y el gobierno vasco que haga todo lo que pueda hacer efectivamente por supuesto que sí el gobierno vasco que haga todo lo que puede hacer las competencias también están perfectamente tasadas y en muchos casos como en este pues no existe pensamos nosotros esa posibilidad por lo tanto comparto alguno de los puntos de esa transaccional que ustedes han firmado como creo que también lo hacen

vasco pero en fin vamos a escuchar primero a ver qué nos dice
el portavoz jeltzale gracias eskerrik asko maneiro jauna

del estado efectivamente este real decreto un real decreto de autoconsumo que el gobierno de españa ha tardado dos años en aprobar por el gran rechazo que ha tenido

nos propuso un texto para proceder a realizar una declaración institucional ya que tras las declaraciones del ministro donde decía que preveía llevarlo al consejo de ministros del treinta y uno de julio

ante la inminente aprobación del real decreto bien debido a la negativa de un grupo aquí en el parlamento vasco no el nuestro esta declaración no se llevó acabo

fieles al compromiso con la plataforma por un nuevo modelo energético nuestra enmienda transaccional

por lo tanto pediríamos la votación por puntos y votaríamos a favor de este primer punto ya nos lo han comunicado por correo electrónico dar las gracias también de antemano tanto a eh bildu como al partido socialista porque sí que hemos intentado llegar a una transaccional desde ayer hemos estado tramitando unos textos y efectivamente bueno al final no hemos llegado a un acuerdo porque teníamos discrepancias en algunos temas que voy a ir pasando a desarrollar

bien el texto este que en julio aunaba un acuerdo mayoritario

un texto que ni tan siquiera se molestó en corregir pese a que se presentó el diecisiete de agosto y hoy es veintinueve de octubre y en el que dice que el gobierno vasco puede hacer todo es decir puede retirar este real decreto que no lo ha hecho

esto lo tienen en la enmienda que presentó eh bildu

hasta ahora gracias a esta transaccional yo creo que eh bildu aquí debería tomar ejemplo

por un nuevo modelo energético que en su texto pide al gobierno de españa al competente en esta revolución eléctrica y no al gobierno vasco

hubiera estado bien que no hubiera parecido que el gobierno vasco

es público y notorio bueno que eso se va a quedar para el histórico bien qué hace este gobierno vasco a favor de las energías renovables y hechos

que como decía en esta actual coyuntura y en un país como el nuestro altamente consumidor de energía sin apenas recursos naturales y con una fuerte dependencia del exterior

y es en el programa de gobierno en su compromiso primero con el empleo y las personas

una estrategia energética a favor de las energías renovables y en este último

es expedientado por bruselas en octubre de este año por la directiva de eficiencia de edificios que se publicó hace cinco años y el gobierno de españa no ha traspuesto al ordenamiento jurídico el gobierno vasco publica el año pasado el decreto dos barra noventa y seis del dos mil catorce de certificación de eficiencia energética de los edificios en marzo del dos mil quince publica la regulación del control y los registros de los certificados de eficiencia energética

para que la propia administración pública sea la tractora y regula

luego la comunidad autónoma de euskadi lo que es la administración pública tractora en el uso de las energías renovables pero de qué más hablamos hoy

y yo creo que aquí también quiero agradecer públicamente a eh bildu y al partido socialista de que no hayan empleado el argumentario que utilizábamos

y nos ponían el ejemplo de la comunidad de murcia de cómo era un referente ya desde el año dos mil seis agradezco que no hayan hecho la mención a este tema

el gran agujero que le iba a meter y yo creo que se metería en un buen lío eh bildu

porque euskadi no es una isla eléctrica euskadi es un país con mucha industria con muchas redes eléctricas y muy interconectado con el norte de españa y francia

el consumo excesivo en un punto demanda más energía y esto ya lo hemos explicado más de una vez la palangana a nivel europeo que

esa necesidad de energía obliga a que rápidamente la energía la podemos consumir ya sea desde

también en este mes de octubre pero hace nueve años lo que le ocurrió a los alemanes cuando decidieron cortar las líneas de producción del rin

cambiaron la hora a la que tenían que cortar ese suministro y cayeron en cadena

desde alemania hasta barcelona pasando por italia

honduras y eso está y lo tienen en cualquier documento

cómo podemos regular desde el país vasco desde el país vasco solo hay una manera de regular y es en el estatuto vasco en el artículo diez

apartado once instalaciones de producción distribución y transporte de energía cuando este transporte

no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra provincia o comunidad autónoma porque como bien saben

las bases de régimen minero y energético son de competencia exclusiva del estado

por lo tanto qué ocurre en euskadi si queremos legislar en instalaciones de producción distribución y transporte de energía pues que tendremos que hacer que este transporte no salga de nuestro territorio de euskadi

esto es posible en euskadi para nosotros no por qué porque dado que somos un país muy industrializado con una red de transporte y distribución muy mallada

cómo se casa todo esto con tener dentro de álava un condado de treviño que pertenece a otra comunidad lo aislamos

no colaboramos con ellos también los aislamos no trabajamos en común y nos beneficiamos mutuamente por tener que cumplir que este transporte no salga de su territorio euskadi y su aprovechamiento no afecte a otra provincia o comunidad autónoma

con unas infraestructuras deficientes también en el sistema eléctrico también les cortamos el suministro eléctrico y los aislamos por cumplir con este transporte que no salga de nuestro territorio de euskadi y su aprovechamiento no afecta a otra provincia o comunidad autónoma y eso interpretando nosotros esto porque el estado español interpreta que es otro país

esta es la única manera de legislar dentro del estado español por lo tanto qué ocurre con la comunidad murciana pues que la comunidad murciana es la única comunidad que sí que tiene una legislación

el favorecer el autoconsumo y favorecer todo esto pero cómo lo hace y lo dice el preámbulo en el apartado ocho si leen la ley en el dos mil seis que dice

cuatro barra mil novecientos ochenta y dos del nueve de junio por la que se aprueba el estatuto de autonomía para la región de murcia en cuya virtud corresponde a la comunidad autónoma

cuando el transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecta a otra comunidad autónoma le suena esto a algo es lo que hemos leído para el estatuto de autonomía y por esto legislan

entonces por qué murcia lo puede hacer pues porque es una sola provincia está en una esquina de la red no limita con otros países como francia con pocas líneas de distribución y transporte eléctrico y toda su industria está en cartagena en el mar donde no existen condados de treviño ni navarras ni iparraldes ni nada de esto bien porque se me agota el tiempo más asuntos sobre la ponencia señora rojo no mienta

que intentamos para la transacción quitábamos lo del inicio

no les gusta y no lo han admitido luego no me diga que es que no quieren ni en el siguiente periodo de sesiones sea y veraz y justa en el punto cinco esperamos al nuevo gobierno yo creo que para

teniendo en cuenta lo que nos ha dicho la señora rojo que bueno el señor sánchez obrará próximamente ya estamos en diciembre yo creo que cargarle

al señor bereziartua con todo este trabajo adicional yo creo que podíamos esperar a enero tranquilamente

y en cuanto a poner más dinero o no poner más dinero precisamente mañana llegan los presupuestos tenemos las enmiendas y tenemos todo pues para seguir esta línea y para

ese es el momento para debatir de dinero eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta efectivamente hablamos de autoconsumo y me gustaría decir qué es el autoconsumo porque

genera su propia energía eléctrica con instalaciones de pequeño tamaño de pequeña potencia generalmente fotovoltaicas

o microgeneración tiene beneficios para un consumidor autoconsumir energía con este decreto sí sí tiene beneficios el autoconsumidor no paga por la energía que autoconsume se ahorra el tener que comprarla a la red eléctrica por lo tanto

asociados a la energía autoconsumida no se ve afectado por los vaivenes o posibles subidas del precio de los carburantes que alteran los precios de la luz y este decreto dos modelos de autoconsumidor autoconsumidor con instalación menor de cien kilovatios y autoconsumidor con instalación mayor de cien kilovatios la instalación menor de cien kilovatios

la energía que no utilice la puede acumular no la puede

pero es que este autoconsumidor tiene dos opciones estar enganchado a la red

el conste es cero no paga absolutamente

nada la energía que produce el sol no tiene impuesto no paga nada porque no utiliza la red

es falso y lo saben pero bueno hay que utilizar las multillas el sol no tiene impuesto luego si está conectado a la red efectivamente no paga la electricidad

no paga ningún impuesto especial de actividad qué paga paga los costes del sistema eléctrico como cualquier consumidor

unos costes verdad pues aquí igual y luego si utiliza el transporte si no quiere acumular la energía que no gasta y quiere

y el transporte que utilice para coger energía de la red si quiere pero desde luego eso creo que es bastante básico la energía no tiene impuesto la energía del sol además sabe usted que el real decreto establece dos tipos de exenciones en relación con los pagos primero para todos los autoconsumidores que tengan contratada una potencia igual o inferior

instalación menor de cien kilovatios

no paga nada es decir no paga nada lo tiene claro tampoco pagan las instalaciones que están exentas

producir electricidad en estas zonas es cuatro veces más caro que

hablamos del otro modelo autoconsumidor con instalación de más de

que autoconsume y vende puede vender y verter el sobrante no puede acumular y como son vendedores

de productores de electricidad lógicamente están haciendo una actividad económica por lo tanto tendrán que

el informe del consejo de estado en relación con este real decreto no solo refrenda el contenido sino que afirma que es conforme al marco legal vigente y desde luego

en todos los aspectos que hacen referencia a lo que el autoconsumidor debe pagar por conceptos de peaje de costes del sistema eléctrico o de cargas por lo tanto algún aval legal tiene eso que dicen ustedes que pasaría si el

no pagara por la red y los servicios de respaldo de no contribuir a financiar el sistema eléctrico sería el resto de consumidores los que veríamos incrementada la factura de la luz para compensar la menor

autoconsumir esto es una subvención encubierta entre consumidores

esta situación nos parece injusta y más aún si tenemos en cuenta que previsiblemente un autoconsumidor es una persona con cierta capacidad económica teniendo en cuenta que ha tenido capacidad para hacerse una instalación

y estaría siendo beneficiado a costa de elevar la factura del resto de consumidores qué pasaría con todos los afectados

creo que se contradicen en sus propuestas hablaban algunos de ustedes de otros países

es verdad que algunos países de nuestro entorno como italia dinamarca o alemania ya hace tiempo

de fuentes de energía renovable y era una vía para desarrollar estas tecnologías y poder alcanzar los objetivos dos mil veinte sin embargo como ya tienen unos años acumulados de experiencia

está revisando la normativa del autoconsumo en parte de alemania también se está revisando la normativa de autoconsumo y por qué

el sistema que tenían un impacto negativo para el sistema al dejar de pagar los autoconsumidores de la red y primas que son trasladadas al resto de consumidores por lo tanto hay experiencia y en base a esa experiencia
estamos legislando mesedez isiltasuna un autoconsumidor conectado
sustituye solamente el servicio de producir electricidad pero no sustituye el servicio de garantía de suministro por lo que debe seguir pagándolo íntegramente si está conectado a la red y su contrato es superior a cien

no hay impuesto al sol no se paga por la energía que produce el sol se paga por garantía del suministro de la energía eléctrica

el resto de meses usted paga un recibo por qué porque usted quiere tener conectada la luz siempre

pero si quiere estar conectado tiene que pagar por lo tanto creo que es algo que es entendible

oiga no si aquí lo que estamos hablando es que el huerto

por qué por mantener los accesos el alcantarillado etcétera me da igual usted lo que quiere es que usted pone los tomates en la huerta y los que le sobran sin saber si están buenos malos

nos los comamos los demás oiga no que no que usted paga la contribución la contribución del terreno lo tenga vacío ponga tomates o no ponga pero va a tener que pagar una contribución y eso es lo que se paga aquí la contribución de los servicios que le prestan para que usted tenga acceso al terreno para que no se le inunde y otras circunstancias

supuestamente a un artículo de este decreto nos parece

oso ondo zeren inguruan erantzun carro jaunari señora lópez de ocariz bien usted ha puesto sobre la mesa una serie de argumentos esos que viene poniendo sobre la mesa el partido popular desde que ya empezó a trabajar el borrador de autoconsumo y ahora ya lo ha convertido en real decreto

y veremos si me los puede contrarrestar usted cuando venga aquí en primer lugar que solo se paga por el fijo y no por la

autoconsumida para aquellos autoproductores y autoconsumidores con una potencia

y también pagar por el boletín de instalador y también pagar por el pago de acometida también pagan por el pago de enganche

a la compañía eléctrica también pagan por el estudio de conexión también pagan dos contadores específicos que se establecen ahora en este real decreto y también paga la inscripción al registro de autoconsumo y usted dirá

pero yo le voy a poner otro ejemplo no compro una placa

el resultado es el mismo que el de la placa porque la placa lo que me hace es que mi consumo energético sea mucho más eficiente uniendo acercando

el frigorífico no tengo que pagar ninguno de todos estos gastos y requisitos administrativos que tengo que pagar con la placa por qué con la placa sí si es lo mismo si estoy consiguiendo el mismo objetivo y encima es que el frigorífico más eficiente me lo está subvencionando el gobierno vasco por qué a las placas sí porque ustedes saben

que esto supone si se aplica como está aplicándose en otros países por ejemplo en alemania

compañías en primer lugar lo que usted no dice también que esa excepción se ha puesto de una manera transitoria

de meterse en una instalación de este tipo de una manera transitoria sin saber cuándo va a recuperar los gastos lo que usted no dice tampoco en ese ejemplo en su huerto de tomates y en su terreno rústico que hay que pagar la contribución es que

aquí le estamos pagando la red a una empresa privada a empresas privadas no a la administración pública una red que ya la estamos pagando en la factura una red que la hemos pagado ya los ciudadanos de sobra y la seguimos pagando en nuestra factura

no una contribución a un ayuntamiento a una administración pública esa es otra de las grandes diferencias por lo tanto

de haber regulado el autoconsumo como se está regulando en otros lugares con la posibilidad de hacer un balance neto en la red y no lo quieren hacer y no lo quieren hacer

eléctricas y para acabar al señor carro qué es lo que usted piensa sobre el autoconsumo le gustaría que en la comunidad autónoma vasca hubiera más autoconsumo eléctrico

que pudiéramos hacer frente a la normativa estatal desde aquí para poder potenciar el autoconsumo me gustaría que me hablara de eso porque sobre el modelo energético

o conocemos ya bastante a fondo cuál es el que usted defiende tendremos tiempo para debatir pero sobre el autoconsumo muy mal el real decreto estatal

no se puede hacer un informe para ver cómo qué influencia tiene a la hora de

las subvenciones que existen hoy en día viendo que va a haber costes añadidos para paliar esos costes no se puede hacer si es lo que le estamos pidiendo

por el respeto que le tengo yo creo que es mejor que no deje usted desde esta tribuna evidenciado cuáles son sus carencias lingüísticas léase por favor en euskera que es en el idioma

la propuesta inicial qué es lo que dice porque dice eusko legebiltzarra jaurlaritzari eskatzen dio

eskatzea es cierto que en castellano hay un error en la traducción son humanos y humanas las traductoras y los traductores y se han equivocado pero usted no deje desde esta tribuna en evidencia sus carencias lingüísticas

repetidos por dos grupos políticos concretamente para evadir el bulto una vez más es el tema de las competencias creo que al final lo más fácil es poner ejemplos claros para que se vea como cuando se quiere se puede

estamos ante ese viejo debate entre las competencias y las incumbencias que es algo que a ustedes se quedan con el tema de las competencias pero parece que lo que no está en la competencia estricta del estatuto tampoco les debe de incumbir

uno el real decreto de dos mil doce que hablaba del tema del repago era algo en lo que el gobierno vasco tampoco tenía competencia y fue el gobierno de patxi lópez el que realizó un decreto para poder actuar en este tema

pero el gobierno socialista intentó buscar una salida para poder evitar el repago relacionado con esto estaba la atención a los inmigrantes irregulares en lo que el gobierno vasco tampoco tiene competencias porque como sabemos el tema de la inmigración depende del gobierno de españa

para poder garantizarle a los inmigrantes la atención sanitaria

por cierto el tribunal constitucional avaló la medida y está en marcha y por lo tanto quedó solucionado quiero decir que cuando se quiere hacer y hay voluntad política para hacerlo

pero es que además les voy a decir otro en lo que ustedes han participado en la votación aunque en fin tengo muchas dudas si se creían lo que estaban votando más allá de que coincidía con un comicio electoral como eran las municipales ley del fracking

que no teníamos competencias para poder actuar en el tema después de un gran debate parlamentario una ponencia que duró

podíamos ir a la ley vasca del agua que en la que sí que tenemos competencia para poder buscar la forma de prohibir el fracking en euskadi votado por el partido nacionalista vasco como digo creo que por presiones electorales se puede o no se puede

quiero decir que las competencias son unas pero es que

la política no hoy toda la vida ha ido o ha intentado ir un paso por delante de los escenarios en los que estamos sujetos hoy en día y creo que la política en esto también ante una demanda social

ante un real decreto que todos décimos que queremos derogar ante eso por qué no se intenta desde el gobierno vasco intentar poner en marcha medidas y políticas claras para poder

mire señor carro ustedes una vez más en el viejo debate de las competencias

en el paso siguiente entonces mi pregunta es a ustedes les incumbe el tema del autoconsumo sí o no

esto respeto a lo que tiene que ver con las competencias lo que tiene que ver con el ararteko pues mire le voy a dejar tranquilo sí pedro sánchez gobernará españa pero es que el ararteko seguirá existiendo gobierne pedro sánchez

el ararteko tiene sus competencias realiza sus intervenciones cuando se le piden o cuando considera que tiene que hacerlo y en fin si vamos a no pedir nada al ararteko porque estamos ante unos comicios electorales pues igual como euskadi está siempre en comicios electorales igual dejemos de pedirle todo no le pidamos nunca nada quiero decir porque eso es en fin es buscar ya no sé

apoyar el punto en el que se les solicita al ararteko un posicionamiento respeto a este tema

pero qué es el inicio del siguiente curso el uno de enero

a la ponencia de energía que el uno de enero trajera las conclusiones de la ponencia

incluso puede ser marzo pero es que los que formamos parte de la ponencia sabemos cómo van el desarrollo de la misma

por eso por ser claros y concisos en la respuesta que yo di en toda esta negociación de esa enmienda decía que era una forma de comprometernos los que formamos parte de la misma

habiendo perdido el tiempo durante tres años porque la ponencia morirá cuando muera la legislatura por lo tanto seamos claros y concisos todos vuelvo a repetir

de autogobierno que para todos quisieran el resto de comunidades autónomas

como para taparnos cuando no nos interesa desarrollarlo y utilizarlo como arma arrojadiza cuando sí nos interesa

en el que se miran todas las comunidades autónomas ahí también utilizamos cuando queremos las competencias de la comunidad autónoma para intentar solventar lo que las competencias de españa no arreglan

pasamos hoja y aparece uno dos tres cuatro

eusko legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio bi puntu y luego aparece en el uno dos tres y cuatro y luego en castellano vamos al castellano

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a qué dos puntos y luego punto uno

entonces pero haber error de traducción

luego las hay que qué hacemos

subvencionarlo luego si tiene algo más de tiempo hace poco el catorce de octubre de dos mil quince se ha aprobado el decreto de veintidós de diciembre el ciento setenta y ocho barra dos mil quince

aquí le habla cómo toda la administración pública tiene que ser pionera y ser tractora de todo el desarrollo de las energías renovables eso para que esté entretenido un rato señora rojo me habla del fracking

durante años ha sido su gobierno cuando

las competencias se lo he comentado con el tema de la legislación que con el tema de la legislación solo hay una manera de legislar y lo ha hecho murcia

desde el estatuto no hay manera de regular esto y ojo que fieles cumplidores ustedes de la legislación estatal

una moratoria de cinco años y qué dijeron ojo que no que eso el constitucional nos sacude no le dejamos y cuando estamos viendo por parte de eh bildu que han sido capaces de hasta reiniciar a lo de ikurriña bai española ez

más cumplidor de las leyes estatales

la verdad es que no me ha dado ningún argumento sólido en los que me demuestre

me dice que tienen que poner contadores hombre es que tienen que poner una instalación en condiciones

no tiene que poner absolutamente nada puede acumular energía por lo tanto

no tiene que poner nada pero si quiere estar enganchado a la red y además las quiere utilizar

es que no sé que nos pide usted una cosa mediocre no sé le creería con mayor rigor me habla de un frigorífico eficiente cómo como los volkswagen o cómo era el frigorífico

señorías estamos hablando de algo muy serio isiltasuna y es que
hay a quienes que les molesta que un gobierno del partido popular

y no señorías en españa por primera vez se regula el autoconsumo y lo regula el partido popular lo hizo en murcia y lo hace ahora el gobierno de españa claro algún problema

decía usted que este decreto es una amenaza y mire amenaza es manipular la información para disuadir a los consumidores y engañarles eso sí que es una amenaza porque sabe usted que no está diciendo la verdad cuando habla de esto

o entonces es que no ha entendido nada pero le considero suficientemente inteligente

qué pulcro en el cumplimiento de la constitución cuando son

y hoy se engancha a la constitución no me lo puedo creer su trabajo en el tema energético es desviar la atención a madrid el desarrollo de las competencias aquí no toca

aquí solo hay una premisa que es no molestar

energético eso es premisa mayor eso sí llamar continuamente insistir

sí al día siguiente de ser aprobada en esta cámara y aquí diciendo lo contrario que tienen mucho respeto por lo que esta cámara aprueba

de cuál es la línea que se puede recurrir eso es lo que hacen ustedes pero qué poca vergüenza no tienen ningún interés

ningún interés este gobierno nacionalista se caracteriza por estar en el gobierno y no gobernar por decir y no hacer por prometer y no cumplir la corrupción empieza por prometer lo que no se puede hacer y eso lo hacen ustedes cada día